gracias señora presidenta eguerdi on guztioi vamos

de su retórica parlamentaria a los hechos a la realidad a lo que realmente tenemos entre manos porque para empezar ustedes piden la retirada de un anteproyecto de ley algunos han hablado de anteproyecto de ley otros han hablado de proyecto de ley

una cuestión formal probablemente y menor para ustedes pero es importante no existe anteproyecto de ley ni proyecto de ley y tampoco existe por supuesto

proyecto de ley ni anteproyecto de ley presentado en el congreso de los diputados no existe

un informe aprobado por el consejo de ministros eso es cierto un informe que está teniendo la lógica tramitación lógica tramitación de este tipo de documentos por cierto un informe

en madrid con los representantes del gobierno del partido popular y que según cuentan algunos en última instancia seguro señor pastor que algún compañero suyo de escaño se lo puede decir en una ejecutiva federal que

retirar ese apoyo pero era un informe que contaba también con un amplio consenso incluso me consta también que el partido

incluso además introduciendo elementos que compartía y que comparte el partido popular y que vamos a garantizar que sea así y es entender y respetar la singularidad derivada de nuestro entramado institucional en el país vasco en todo caso de nuestro entramado institucional

las diputaciones forales pero eso es la realidad y es un informe que está

ampliado y debatido cuál es la realidad

tenemos en españa un entramado público desmedido que hay que reordenar y que hay que mejorar

hay un entramado institucional insostenible tal y como está diseñado

que no hemos tenido el valor y no hemos tenido la capacidad desde luego no la capacidad de consenso ni la capacidad de reflexión para analizar

y treinta años después es absolutamente necesario hacerlo es necesario hacerlo porque hay una situación de crisis económica que hace insostenible el sistema eso es cierto

los tiempos han cambiado porque ni la sociedad ni las demandas de los ciudadanos son las mismas hoy que eran treinta años y la realidad en la que hacemos política

tampoco es la misma hoy que hace treinta años si ante una modificación planteada con estos criterios

son el trazo grueso de ustedes se quieren cargar no sé qué servicios ustedes quieren privatizar eso demuestra el por qué somos incapaces de profundizar una reflexión que nos lleve a modificar el entramado administrativo institucional para ser más eficaces y

al ciudadano pero eso es un reto que tenemos que abordar y es verdad que lo tenemos que abordar en un contexto complicado económicamente pero no es menos cierto que independientemente del contexto económico en el que hacemos política y nos toca gestionar es una obligación que tenemos porque insisto el mundo ha cambiado

señor maeztu o señor pastor y tenemos dos opciones

ensimismados con nosotros mismos y con la comodidad que nos proporcionan no movernos

o afrontar este reto de introducir alguna modificación que mejore el sistema y por lo tanto que mejore el servicio que prestamos al ciudadano y es que además nos encontramos también con otra realidad que nos supera y es que esto es una obligación impuesta por la unión europea

de la unión y les exige también que su administración sea más eficaz que gestione mejor los recursos que no incurra en déficit en ninguno de sus escalones administrativos y políticos que no incurra el déficit la administración general del estado que no lo haga

las administraciones locales estamos obligados a afrontar una modificación una reforma una reestructuración de nuestro sistema político competencial derivado también de una obligación impuesta por la unión europea

y tenemos porque así no lo impone que eliminar duplicidades

como acción también política hemos decidido yo creo que hemos decidido todos salir de la crisis al menos eso es lo que décimos en público

y salir sacar a nuestro país de la crisis y la realidad es que a los ciudadanos ya les hemos pedido demasiados esfuerzos

no hay más ahora nos toca a los políticos

para ser más eficaces más austeros prestando el mismo servicio un servicio de calidad

surge es qué les impide a ustedes afrontar con rigor y con seriedad y con crudeza esta reflexión

qué les impide reformar la administración aun a riesgo de que algún partido político algunos partidos políticos o algunos políticos puedan perder

algún tipo de privilegio o de prebenda o de poder que retos

afronta la realidad del informe que está escrito y que está siendo por cierto ampliamente modificado porque yo les puedo confesar una cosa hay un informe cuando fue aprobado por el consejo de ministros

se ha reformado de una manera importantísima se hablaba de supresión de concejales

porque es verdad que a mi juicio un error de aquel informe inicial podía ser que proyectará la idea de que el problema

ese es un problema yo discrepo profundamente de eso el problema no es que haya concejales que por

no cobran sueldo y ustedes lo saben con lo cual ese no es un problema financiero de la administración

ha desaparecido también es cierto que se hablaba de la supresión de mancomunidades eso se ha eliminado también es decir estamos hablando de algo todavía

algo sobre lo que no podemos pedir la retirada porque no existe materialmente y algo sobre lo que todavía

pero sí es cierto que hay un trabajo para intentar racionalizar la administración eso sí es cierto qué retos contemplaba el informe clarificar competencias obligatorias es decir qué es lo que se tiene que hacer y quién lo tiene que hacer ustedes saben que en españa

millónes de euros por diversos conceptos pero las comunidades autónomas deben a la administración local nada más y nada menos que mil cuatrocientos millónes de euros fundamentalmente por competencias

y no abonadas por las comunidades autónomas competentes en la materia y eso hay que solucionarlo

qué aborda también ya se ha comentado también resolver el gasto duplicado y las competencias impropias

y hay que abordar también asegura también la gestión financiera de los municipios es cierto para los casos en los que se firmen convenios con otras administraciones y no sean pagados y van a tener obligación

y tendremos que resolver en euskadi cómo se hace esto con las diputaciones forales también es cierto

esos impagos derivados de un incumplimiento de los convenios se profesionaliza la gestión pública se pone en valor el ejercicio de la política y además se clarifica también para que aquí cada cual no haga de su capa un sayo

de sueldos para concejales y para corporaciones locales

y además tiene que haber un equilibrio entre las administraciones no puede ser que aquí cualquiera haga lo que le dé gana y el alcalde de turno de no sé dónde se imponga un sueldo por encima de un secretario de estado que va a ser el tope eso

va a poder disfrutar cualquier persona que se dedica a la política en la administración local también que no es poco se implementa un modelo de gestión también por resultados

un modelo de gestión que implementa también evaluaciones en la gestión no tanto de los ayuntamientos o diputaciones

esa maraña de sociedades públicas que escapan muchas veces al control político

y se introducen elementos de evaluación porque no vale también aquí que cree una sociedad pública que gaste lo que tenga que gastar que no da cuenta a nadie que es deficitaria y que engorda el déficit al final

y es cierto se introducen elementos de control y de gestión y de máxima transparencia también y

según el último informe la previsión de ahorro hasta el dos mil quince si fuera

de llevar adelante el futuro proyecto de ley convertido en ley a finales de año

en un ejercicio de contención de la administración solo de contención de la administración

y termino diciéndoles compartiendo con ustedes señorías que necesitamos

que profesionalice el ejercicio de la política que profesionalice la gestión que introduzca elementos de rigor también y de control y de austeridad presupuestaria y por eso además los ciudadanos estamos convencidos de que tienen todo el derecho a exigirnos eso y a exigirnos que

y que la administración haga igual que los ciudadanos que no gastan lo que no tienen cuando gastan lo que tienen

ha solicitado al gobierno del partido popular que reconsidere esta iniciativa y que no aplique la reforma de la administración local en euskadi porque el anteproyecto de la ley

una grave injerencia del principio de autonomía local la reforma además no distingue entre las administraciones locales que han gestionado con solvencia y eficacia y aquellas que no lo han sabido hacer nuestros ayuntamientos presentan una situación saneada

presupuestario y los ayuntamientos vascos no hemos contribuido para nada al pésimo estado de las finanzas públicas del estado

relativos a tres magnitudes económicas el gasto municipal per capita de los municipios vascos es superior al del resto de los ayuntamientos del estado

medio por habitante más elevado y en cuanto al remanente de tesorería los ayuntamientos de euskadi ocupan la primera posición con una ventaja más que considerable respecto de los ayuntamientos que ocupan

esto nos demuestra que con esta reforma se nos quiere hacer pagar a justos por pecadores

he llegado a pensar que con esta reforma lejos de reconocer la mayoría de edad de nuestros ayuntamientos cuestión que creo que todos coincidimos aquí

una cuadrilla de imprudentes de manirrotos y que por tanto debemos estar sujetos en todos momento a la tutela y fiscalización del interventor

una se queda perpleja ante la mutilación de competencias que va a suponer esta reforma

por los municipios o por las mancomunidades la calidad de los servicios va a dejar de existir para ser sustituido exclusivamente por el criterio economicista y en consecuencia los ciudadanos van a percibir peores servicios públicos eso es lo que queremos

yo al menos me esfuerzo todos los días en cumplir con nuestro programa electoral

qué pasa con las mancomunidades y con los consorcios a través de las mancomunidades se busca la eficacia de los servicios públicos

es lo que nos permite por ejemplo que la señora de dima reciba los mismos servicios sociales que la señora de bilbao y todo ello gracias a través de la mancomunidad

la intervención a la que van a estar sometidos es compatible con el principio de autonomía municipal pues indudablemente en el caso de los funcionarios de habilitación nacional se obvia cualquier referencia a la lengua propia de la comunidad quiere eso decir que el conocimiento del euskera no será un requisito para el desempeño de los puestos de la más alta calificación

quiere eso decir que el pleno municipal no va a decidir sobre los requisitos de las rpts pues nos parece una ingerencia inaceptable

nos parece totalmente desproporcionado el papel que se otorga a los interventores respecto al control económico financiero de la actividad municipal siendo el pleno el órgano de máximas significación representativa en la función fiscalizadora se llega a equiparar al interventor con el pleno municipal

de remisión de la resolución municipal al ministerio de hacienda dónde queda la autonomía municipal dónde la capacidad de autoorganización

dónde la representatividad democrática de quienes tenemos la obligación y la responsabilidad de gestionar los asuntos cuyo logro redunden en beneficio de nuestras poblaciones

según la doctrina la autonomía local ha de ser entendida como un derecho de la comunidad local

a través de los órganos propios en el gobierno de la administración de cuantos asuntos les atañen pues bien del texto ha desaparecido de una manera significativa el principio de participación ciudadana lo que denota un sesgo puramente

en que se basa toda la reforma en detrimento del desarrollo del principio democrático por todo lo expuesto el gobierno vasco ha instado al ejecutivo español

no lo haga que no aplique la reforma de la administración local en euskadi y que respete la singularidad de nuestro entramado institucional tenemos numerosos ejemplos en los que el peculiar sistema foral de régimen local ha sido reconocido en diferentes leyes estatales

la ley de contratos del sector público en el estatuto básico del empleado público etcétera

una propuesta de resolución cuyo tenor literal dice así

refleje expresamente la singularidad del entramado institucional vasco contó con el voto favorable de todos los partidos menos evidentemente

guztiak además tenemos que recordar que hemos constituido una ponencia en esta cámara para analizar nuestra arquitectura institucional y evidentemente

ambas cuestiones todos coincidimos y así lo recogemos en la enmienda transada que el gobierno debe aunar un amplio consenso político e institucional

requiere su tiempo entendemos que el plazo de doce meses es un plazo razonable

el parlamento estableció un plazo de quince meses para presentar este proyecto me hubiera gustado finalizar aquí mi intervención congratulándonos por el consenso alcanzado pero señor pastor tal y como le

en relación a los plazos y a cómo trajeron ustedes el proyecto

únicamente recordarle que ustedes tardaron doce meses en remitir el proyecto a la cámara una vez de que habían recibido las bases de eudel

desde que la consejera había prometido el proyecto y otra cosa que también me gustaría destacar es cómo trajeron ustedes el proyecto de la ley a este parlamento

un proyecto de estas características sin consensos políticos previos y sin consulta con las diputaciones y no se lo digo yo se lo dijo en su momento la señora garrido quien entonces eran sus socios precedentes y además como le dije en su día esta ley la trajeron sin los informes que eran

ha hecho usted de referencia a la propiedad intelectual de la ley en todo caso usted no se puede arrogar esa propiedad intelectual

las vascas y los vascos porque en definitiva somos los que hemos pagado la ley indudablemente este gobierno tiene puesto

somos conscientes de la necesidad de esta ley y por eso el gobierno del señor urkullu cumplirá el plazo y traerá la ley consensuada

muchas gracias presidenta efectivamente en estas iniciativas

coincidencia básicamente coincidían en pedir al gobierno de españa la retirada del anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local

municipal finalmente se ha firmado una transaccional con el grupo nacionalistas vascos pidiendo básicamente esto es cierto

el anteproyecto no ha sido presentado no sé si es un anteproyecto o un borrador de anteproyecto pero en todo caso tiene razón el señor semper en que

llevado al congreso de los diputados y por lo tanto nosotros no vamos a entrar en el juego nos parece ciertamente poco productivo

al congreso de los diputados y que cuando llegue lógicamente debería ser debatido para empezar y por lo tanto ya les anuncio que nosotros no vamos a votar a favor de esa enmienda de transacción voy a decir algunas cosas que seguramente

son ciertamente interesantes más allá del trazo más o menos grueso mantenido por algunos portavoces

efectivamente más allá de criticar lo que plantea este

decir que algunas cosas que plantea están bien quiero exponer de manera clara qué es lo que upyd considera que españa es decir los ciudadanos españoles y también los ciudadanos vascos necesitan para modernizarse internamente y salir de la crisis cuanto antes qué es aquello que efectivamente necesitamos para salir cuanto antes de la crisis modernizarnos y por lo tanto dar una

el debate no es defender la foralidad el debate no es defender las diputaciones provinciales o las diputaciones forales el debate no es defender la singularidad

y de los representantes políticos tiene que ser defender los intereses de los ciudadanos y darles el mejor servicio posible

españa es decir los ciudadanos españoles necesitan a día de hoy cambios radicales en el estado autonómico actual en el estado autonómico que padecemos por así decirlo y nosotros pensamos que españa necesita

en profundidad del estado autonómico y el objetivo debería ser conformar un verdadero estado federal simétrico y cuando digo simétrico digo simétrico

un estado autonómico simétrico dentro de una europa federal donde las diferentes comunidades autónomas

no sé si esto es café para todos pero es lo que pensamos que es mejor para el conjunto de los ciudadanos y donde el estado central se reservaría determinadas competencias

fuera llevada a cabo por las comunidades autónomas es decir necesitamos una reforma en profundidad de la constitución española

igualdad y el máximo bienestar posible para el conjunto de los ciudadanos esa es

tenemos una estructura de estado absolutamente elefantiásica inviable que provoca hipertrofia administrativa y despilfarro

en lugar de tratar de defender los intereses partidarios de unos partidos políticos u otros en general los partidos políticos mayoritarios y desde luego

de la administración local lo cierto es que el gobierno del pp anunció por fin su reforma de la administración local

tiene en nuestra opinión dos graves problemas por una parte un diseño poco ambicioso y en algunos aspectos contraproducente y por otra lo que es ya una constante en el ejecutivo del señor rajoy la falta de credibilidad que afecta a algunas propuestas que podrían llegar a ser positivas podría enumerar

qué es aquello que nos parece negativo de este anteproyecto pero

entendemos que es una propuesta que disminuiría la pluralidad de los municipios cuando se plantea o se planteó en su momento la supresión de sueldos de concejales entendemos que como consecuencia de ello personas muy preparadas que han venido trabajando de manera seria y honesta

se propone al menos supuestamente una clarificación de competencias que es una buena idea

las competencias impropias que es una buena idea pero por otro lado en este anteproyecto falta clarificar las competencias también de las comunidades autónomas y del estado

la posibilidad de intervenir los municipios trasladando determinadas competencias a las diputaciones provinciales cuyos miembros no son elegidos democráticamente y esto significa una degradación de la democracia y la posible y consiguiente privatización de servicios

desde luego se necesita un baremo o una tabla de sueldos públicos no es normal que un alcalde de una ciudad media

esto es un disparate y hay que reformarlo y por lo tanto

miren de este anteproyecto hay algunas cosas que están bien y esta en concreto pues puede estar bien en todo caso ya digo que este anteproyecto en general no nos gusta porque no abarca lo que debería ser la necesaria reforma del estado autonómico que necesitamos

también se necesita en todas estas reformas absolutamente indispensables proceder a una fusión

más pequeños al margen de los intereses partidarios de los diferentes partidos políticos existe a día de hoy un consenso bastante amplio entre los técnicos en la materia

habitantes por tanto y en nuestra opinión lo que verdaderamente supondría una revolución sería fusionar los ayuntamientos más pequeños

los mejores servicios posibles a los ciudadanos una vez producida esa fusión que upyd propone y defiende las diputaciones provinciales

sus defensores se trata de una administración muy poco eficiente y que presenta un déficit democrático al no ser sus representantes elegidos de forma directa y lógicamente

provinciales en euskadi obviamente las diputaciones forales son distintas pero también para euskadi defendemos la misma propuesta que para el resto de españa fusión de municipios

y clarificación de competencias la reforma del gobierno lo cierto es que potencia a las diputaciones provinciales y esto nos parece un grave error por todo lo que les estoy diciendo tal como ha dicho semper

para el período dos mil trece dos mil quince upyd

estima que una reforma a fondo incluyendo la fusión de municipios y la eliminación de diputaciones podría suponer reducir el gasto

municipal no se asusten ustedes es un proceso que ha sido llevado a cabo en todos los países europeos en todos los países de nuestro entorno

sin ningún tipo de problema no podemos olvidar que la organización municipal y provincial de españa tiene su origen en el primer tercio del siglo diecinueve han pasado dos siglos señores y señoras parlamentarios y algunas cosas siguen ni siquiera la constitución de mil novecientos setenta y ocho introdujo cambios en la estructura local ya es hora de que nos modernicemos como he dicho antes

el mantenimiento de los ayuntamientos incluso de los más pequeños y de los más inviables porque sí el objetivo tiene que ser dar el mejor servicio posible al conjunto de los ciudadanos conjunto de los ciudadanos vascos y por lo tanto estas son nuestras propuestas y las décimos siempre sin ningún tipo de complejos y con toda la claridad del mundo en fin ya upyd ha defendido en alguna otra ocasión la necesidad de proceder

lo hicimos de la mano de eusko alkartasuna que parecía que veía con buenos ojos esto de dar los pasos necesarios para llevar acabo una fusión municipal es

tiene a día de hoy dos millónes de habitantes tiene doscientos cincuenta y uno municipios tres diputaciones forales un gobierno vasco decenas de sociedades públicas administración central esto es un absoluto disparate esto es absolutamente inviable y por lo tanto necesitamos reformarnos necesitamos modernizarnos ya digo como han hecho en otros países europeos sin ningún tipo de problemas se han producido en las últimas décadas fusiones municipales en alemania donde han pasado

en dinamarca que ha suprimido el noventa por ciento de los municipios o de los ayuntamientos el bélgica que han reducido de mil trescientos a seiscientos en holanda en suecia se ha hecho y no pasa nada no hay ningún tipo de problema y por lo tanto esto es lo que proponemos por lo tanto y termino necesitamos reformular y refundar el modelo autonómico para hacerlo necesitamos suprimir las diputaciones provinciales necesitamos fusionar ayuntamientos y necesitamos una nueva distribución de competencias algunas competencias deberían ser trasladadas a europa otras deberían ser trasladadas a las comunidades autónomas y otras deberían ser trasladadas a los ayuntamientos
para que las ejercieran con todas las garantías maneiro mesedez bukatzen joan
termino y una reducción drástica de toda esa panoplia de entes públicos que solo han servido para que los partidos políticos enchufen a sus amigos esto es lo que debe hacerse para dar el mejor servicio posible a los ciudadanos

defender a los ayuntamientos la foralidad o el entramado institucional y mucho menos los intereses

de los partidos políticos mayoritarios sino defender a los ciudadanos y para defender a los ciudadanos lo que se necesita a día de hoy es una reforma en profundidad del estado y desde luego también una reforma de la administración local esto es

gracias presidenta mire señor semper usted ha empezado justificando

es una gran mentira la unión europea no nos obliga a cerrar ayuntamientos ni a despedir funcionarios

políticamente ni acatarles la capacidad de representatividad que tienen de una parte de la sociedad española la unión europea obliga una racionalización de las administraciones

por lo tanto no me diga usted que lo que quiere hacer el partido popular lo hace porque se lo manda la unión europea porque no es cierto porque los deberes se pueden hacer bien o mal

ese llamado informe que ustedes plantean y con el que es verdad que empezamos a negociar con ustedes y que afortunadamente dejamos de hacerlo

pues plantea un horizonte muy preocupante para los ayuntamientos y no estamos hablando de defender concejales ni de defender instituciones públicas que también porque cuando se oye hablar a representantes del pp de las administraciones públicas da la impresión

de la sociedad española y que tiene una función representativa y política tan importante o más que la de administrar los recursos de los ciudadanos españoles y eso

perfectamente en cuenta no se puede hacer una especie de dicotomía entre la sociedad y las instituciones públicas y justificar todo en base a los intereses ciudadanos o no son ciudadanos los doscientos cincuenta mil empleados públicos que se van a ir a la calle con la propuesta que ustedes hacen sí

de eliminación de ayuntamientos y de regulación de otros provoca el despido

y ojalá no lo veamos pero también son ciudadanos y desde luego nosotros no vamos a entrar en su criterio de hacer del déficit cero una especie de sacrosanto tótem

porque habrá que recordar que es la administración local en el conjunto de españa la que menos aporta al déficit del estado y por cierto la que mejor se ha aplicado a hacer los deberes

por cierto regidos por alcaldes del partido popular no son los ayuntamientos los que están aportando ni mucho menos la mayor carga a la deuda del país en ningún caso de ninguna manera y en cualquier caso si es tan importante el déficit cero por qué están ustedes reclamando desde el gobierno central que se amplíe el plazo para cumplir el criterio de déficit que marca la unión europea del primero seis y pico

que se flexibilice y qué quiere que le cuente de las comunidades autónomas del pp que sobrepasan con creces el límite establecido

de cierto privilegio para seguir manteniendo esa situación por lo tanto quienes están cumpliendo mejor que nadie entre las administraciones son precisamente la administración local

la carga de la prueba donde no corresponde y en cualquier caso señor semper

supongo que cuando pase de ser informe a anteproyecto pedirá la retirada como estamos pidiendo nosotros ahora si quiere usted utilizar ese argumento

trataba de diferenciar y me parece muy bien lo público de lo privado la actividad privada de la sociedad con lo público pero

son ustedes o no es mezclar lo público y lo privado que el ayuntamiento de madrid

privaticen servicios que luego ellos gestionan a través de determinadas empresas de los que ellos forman parte eso es mezclar lo público con lo privado señor semper y brevemente para la señora otadui no se moleste usted también ya sabemos

un poquito de autocrítica porque si la ley municipal el proyecto de ley municipal llegó con retraso a este parlamento

originalmente diputados generales por qué se dedicaron a torpedear permanentemente la tramitación del proyecto pregúntele a eudel por qué pidió reiteradamente prórroga tras prórroga

pregúntele usted a las diputaciones forales y al partido nacionalista vasco que lo inspiró por qué recurrió a la comisión arbitral para volver a intentar retrasar nuevamente el proyecto y en cualquier caso nosotros no queremos hacernos partícipes de ningún

es que como era un proyecto de gobierno en cualquier caso de uno o de otro de gobierno el actual gobierno no lo hiciera suyo eso es lo que nos llamó poderosamente la atención

no entendíamos por qué ustedes no lo recogieron encima de la mesa y al menos lo plantearon como documento de trabajo porque la contestación del gobierno es que no había proyecto de gobierno y que había que esperar

en madrid y luego daban por descartado que aquel proyecto del gobierno vasco no lo consideraban como tal por lo tanto cada cual que asuma su propia responsabilidad se lo sigo sin acritud como se solía decir anteriormente porque en cualquier caso

positiva de este punto que es que vamos a ser capaces de aprobar una enmienda transaccional que esperemos

dentro de un año cuando el gobierno cumpla el compromiso que aquí se adquiere por parte de los tres partidos políticos que firmamos la transacción y podamos entrar a debatir
de verdad la ley municipal y en esta legislatura se pueda aprobar eskerrik asko pastor jauna

sí que es cierto que no es el único documento dos textos como mínimo ha habido pero con su exposición de motivos su articulado sus disposiciones transitorias como anteproyecto de ley pero

llámele como quiera lo que queda claro es la voluntad del partido popular de seguir recortando

de que lo que hay que hacer es mejorar nuestro entramado institucional y lo quieren esconder detrás de esa frase los recortes que quieren aplicar y además para argumentar

eso lo que dicen es que hay que dejar de apretar la teta de la vaca literalmente así lo ha dicho intentando

de nuestras posibilidades y eso lo dice el representante de un partido que lidera el ranking de imputados por corrupción

que no tienen aviones y eso lo dice el representante de un partido que hace estaciones de ave sin pasajeros por lo tanto que vengan aquí a darnos lecciones a querer decirnos que lo que hay que hacer es mejorar nuestro entramado institucional es mentira

todos y todas por encima de nuestras posibilidades es mentira algunos

de todas nuestras posibilidades pero no intentan repartir su responsabilidad a todos los demás

sí que es cierto que la unión europea les obliga porque eso que ustedes llaman unión europea son los mercados son los bancos alemanes que quieren cobrar lo que han prestado

que cobrar claro que lo hacen pero no es que quieran ustedes

duplicidades pero no le reconocemos que ustedes lo quieran hacer ahora bien si hay que decir algo sobre el entramado institucional

es aquí nosotros decidimos y nosotras decidimos cuál es el entramado institucional del que nos queremos dotar

que sí se ha desarrollado la ley de territorios históricos pero no la ley municipal

que es el momento de poner en marcha el debate sobre la ley municipal más que poner en marcha el debate que lleva debatiéndose más de treinta años plasmarlo en un texto llevarlo a los ayuntamientos y empezar a poner en el papel

en rankings si quiere establecer el debate en eso términos vamos a ello

que su cabreo sobre eso no supera el mío y la censura que yo puedo hacer y que nosotros podemos hacer de esa situación no la supera usted pero hablemos de rankings ya que usted habla de recortes democráticos quizás nosotros tengamos

y viene aquí a hablarnos de democracia me gustaría usted que fuera igual de crítico

y usted como aquellos que dentro de su partido o que amparados por su partido

hágalo y luego hablamos de tú a tú en cualquier caso señora otadui gestionamos tan bien en euskadi que tenemos

de maravilloso autogobierno hemos sido incapaces de sacar adelante una ley municipal y lo he dicho

es una autentica vergüenza para cualquiera que haga política en euskadi en este parlamento

una ley municipal o de financiación de los entes locales de respuesta a la financiación deficiente de los entes locales es una responsabilidad de todos pero principalmente suya y de estos señores que han gobernado solos en coalición como medio pensionistas durante estos treinta años interrumpidamente partido socialista y partido nacionalista vasco con diversas fórmulas y entre unos y otros han sido incapaces de traer a esta cámara

y ahora el problema es que hay un informe danzando por no sé donde no sé qué sitio que nos afecta pero aquí nadie asume ninguna responsabilidad pero aquí nadie es capaz

que han gobernado ustedes que están pidiendo que se retire señor pastor algo que no existe

presentar y van a votar ustedes van a votar conscientemente algo que es de ejecución imposible porque van a votar ahora un texto que pide la retirada de algo que no existe y lo van a hacer y se van a quedar tan anchos y no son capaces de rectificarlo

y de financiación ustedes que han cogobernado y han gobernado esta tierra durante estos treinta tantos años

a ver quién es el autor intelectual a ver quién tiene más culpa menos mal que

esto es de vergüenza el ejercicio que ustedes han hecho aquí en esta cámara de culparse recíprocamente de quién tiene más culpa y quién es autor intelectual

de un borrador de ley municipal este es el resumen de su intervención señor pastor

claro señor pastor yo no he justificado el informe lo que he intentado ha sido explicárselo porque he visto que tenía lagunas importantes

he intentado aportar rigor frente al discurso de trazo grueso tan generalista que se pierde en la nada y que no concreta y claro

lo público con lo privado y es cierto que ejemplos pocos edificantes también han tenido dirigentes de mi partido en otros lugares y le vuelvo a insistir

a usted se le ha olvidado por ejemplo la confusión de lo público y lo privado de los eres de andalucía por ejemplo es que aquí se ha hablamos con rigor hablamos de todo

hacer política de esa manera del y tú más es también algo

y hasta aquí mi tú más pero

hablar sobre la administración pública es como si esto lo pagara el viento esas expresiones que a usted le sonará esto los ayuntamientos el entramado institucional la administración pública

la obligación de que el entramado institucional sea eficaz porque gestionamos dinero que no es nuestro que es de la gente que paga con sus impuestos que le cuesta pagar con sus impuestos

de que haya administraciones ineficientes no nos lo podemos permitir

con un mínimo de seriedad y de rigor existiendo duplicidades en el ejercicio de las competencias de los ayuntamientos no podemos hacerlo y tenemos que abordar ese reto de una vez por todas eso es lo que intenta hacer el gobierno de españa seguro que con cosas que serán mejorables y

pero no podemos estar un minuto más despilfarrando el dinero que la gente paga con sus impuestos no lo podemos hacer

o reformar o abordar con rigor con responsabilidad con seriedad una reforma integral de la administración

la reforma de la administración planteada por el gobierno no tienen no sé qué intereses ocultos para favorecer a los mercados ya la pirueta triple salto mortal del señor maeztu

y ustedes saben igual que yo que el gran reto de la administración pública en españa es dotar de una financiación adecuada a los entes locales de la que hoy carecen ustedes lo saben el gran reto de la administración pública en españa

duplicidades la gestión de competencias que no le competen a los ayuntamientos fundamentalmente a los ayuntamientos

y cuando llega el debate cuando llega el momento de la verdad hay miedos no hay valor para hacerlo
y recurrimos a las frases gruesas a los mercados al no sé qué pero hay que hacerlo semper jauna amaitzen joan mesedez

lo que se debe de acabar es el chollo del despilfarro y el chollo de la ineficacia eso sí se tiene que acabar

lo haga alguien que comparta carne conmigo carne con ustedes con ustedes o con ustedes

se tiene que acabar muchas gracias eskerrik asko

que el comité de las regiones critica en un dictamen la supresión de municipios y por qué porque implica una merma

y a juicio del comité de las regiones debe considerarse con suma prudencia esta cuestión

una vez más en este tipo de debates upyd es el único partido político que además de criticar al resto plantea propuestas concretas y quizá

no tienen ustedes mucho que decir o no saben qué decir a todo lo que nosotros hemos planteado el señor semper de vez en cuando me miraba hacia arriba parecía como que iba a entrar

para decir que la fusión de municipios es mejor hacerla de manera prudente como ustedes quieran con toda la prudencia del mundo pero la fusión de municipios hay que hacerla y hay que plantearlo y no solo la fusión de municipios sino todas estas medidas sobre las que ustedes no quieren hablar

no sabemos que piensan da la sensación de que ustedes siguen siendo partidos políticos tan conservadores como hasta ayer pretenden que todos siga como está

todo está cada vez peor y ya va siendo hora de que nos modernicemos y tomemos las medidas necesarias para salir de la crisis y yo insisto más allá de los trapos sucios que ustedes han lanzado la cabeza más allá de criticar los casos de corrupción

yo creo que estaría bien hablar también de estos asuntos concretos y han tenido ustedes

pero no han querido es posible que nosotros traigamos este debate en forma de proposición no de ley para saber al menos ustedes qué piensan sobre la reforma del estado autonómico en lo que no entra el actual gobierno y no entra el partido popular sobre la necesidad de

donde no entra el partido popular ni el partido socialista ni ningún otro partido político sobre la supresión necesaria y perfectamente democrática muy democrática de las diputaciones provinciales

cuyos miembros no son elegidos democráticamente y que son utilizados por los partidos políticos

nadie da el paso de proponer la supresión de las diputaciones provinciales y me refiero en este caso de las diputaciones provinciales aunque también nosotros defendemos la supresión

realizar esta propuesta la supresión de las diputaciones provinciales nunca más se supo usted señor pastor

no ha tenido tiempo fusión de municipios eliminación de duplicidades triplicidades derroches y despilfarros

lo que nosotros necesitamos aunque a ustedes les dé pereza intelectual hablar sobre la materia y prefieran dedicarse a lanzarse trapos sucios a la cabeza o exponer los casos de corrupción que son muchos y variados del contrincante político todo esto es lo que necesitamos y antes no lo he dicho pero necesitamos también ley municipal una necesidad evidente e indudable para los ciudadanos vascos una ley que otorgue a los ayuntamientos competencias claras

financiera en plena contradicción con las tan habituales políticas clientelares y con la dependencia financiera de los ayuntamientos esto es lo que necesitamos

para modernizarnos y para salir de la crisis nada más y muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna amaitu da eztabaida eta

eskerrik asko presidente andrea vuelve una vez más a este parlamento el nacionalismo a plantear el tema de las selecciones vascas esta vez por vía de eh bildu también con enmienda del pnv pretenden que se dé

o contra la selección española en distintas materias deportivas con esto demuestran que quieren también con el deporte o mejor dicho utilizando el deporte para lo falso para lo pequeño para lo divisor para lo aislado

esto de la selección de euskadi si no es para un ámbito autonómico

no es acorde con la historia del país vasco y no es una buena realidad para el propio deporte vasco puedo demostrar y así lo voy a hacer que lo de una hipotética selección vasca oficial que acabase con la participación de los deportistas vascos en la selección española

desde un punto de vista político desde un punto de vista de tradición vasca y tampoco es real de un punto de vista deportivo es un imposible contraproducente por qué no es verdad desde el punto de vista político porque no encaja en el marco político y legal que los vascos nos hemos dado libremente en términos generales la participación de la selección vasca en una confrontación deportiva internacional en el que están

en este caso la española es desde un punto de vista jurídico inviable se opone a ello el vigente marco de organización política derivado de la constitución de mil novecientos setenta y ocho

existente en la materia así lo dice y también las normas de carácter deportivo como ejemplo y para no hablar por hablar les puedo citar el artículo treinta y dos punto uno de la ley diez barra mil novecientos noventa del deporte

de sus miembros en actividades o competiciones deportivas oficiales en el ámbito estatal o nacional las federaciones deportivas de ámbito autonómico deberán obligatoriamente integrarse en las federaciones deportivas españolas correspondientes

es un reflejo del marco legal que en el caso de las relaciones internacionales son competencia exclusiva del estado y además no solo por legislación del estado sino por ejemplo

de fútbol en el mundo solo tiene una exclusión puntual y según la tradición

muy antigua del reino unido no hay ninguna selección más en ese

que hasta en cuatro sentencias avalan que no existen la posibilidad para estas selecciones troceadas el mejor ejemplo de lo que les digo del constitucional es la suspensión indefinida

de la ley vasca del deporte de mil novecientos noventa y ocho que pretendía promover la participación de las selecciones vascas

en competiciones internacionales oficiales no solo no tiene viabilidad legal es que les puedo decir que tampoco tiene nada que ver ni con lo vasco ni con la tradición vasca podía decirles aquí ahora que la verdadera historia del país vasco

es la de conformar desde hace siglos una nación española en la que los vascos hemos jugado un papel importante siempre

que la verdadera tradición vasca de los deportistas de álava

españolas puede también que ahora con la costumbre que tiene el nacionalismo a o b de inventar la historia

tuvimos selecciones antiguamente y que vino el franquismo y las quitó pero eso sería

para que se hagan una idea les puedo poner como ejemplo el fútbol y decirles

hace un siglo antes del franquismo ubera

ya jugaban al fútbol en la llamada roja vascos como aedo antero ayestaran bienzobas emilín gamborena gaizueta ipina juanín kiriki laca lafuente lecue mariscal

peña regueiro roberto rous sabino sagarzazu trino travieso

o zubieta hace más de cien años antes

estos ya jugaban en la selección española de fútbol esa es

y la que hay que citar cuando se habla de selecciones nacionales lo suyo

lo que ustedes proponen no es la tradición deportiva vasca no es la cultura vasca tampoco es

porque no lo permiten pero es que además lo que ustedes plantean es un sin sentido deportivo de hacerse

señores y señoras de bildu y del pnv

saldríamos perdiendo

los aficionados vascos al deporte no solo

una selección nacional que obtiene logros indiscutibles sino que sería un desastre porque se acabaría con la participación

de hélice las selecciones vascas que ustedes quieren y ustedes quieren

de que se acabase la liga española de fútbol la acb y a asobal y quiero

y los ciudadanos escuchen lo que les voy a decir aunque les parece gracioso graciosa su iniciativa más que mi respuesta de conseguir los dirigentes nacionalistas

vascas eso conllevaría que en disciplinas como el fútbol

por los veinte primeros equipos de este momento aunque me pese decirlo real sociedad athletic alavés eibar barakaldo

y la cultural de durango que son por ese orden aunque a mi me pese en este momento los veinte primeros equipos de fútbol vasco

es muy respetable el izarra el bermeo o

prefiero ver en mi localidad de san mames los domingos al valencia al sevilla

que eso prefieren la inmensa mayoría de los seguidores del athletic y la real por eso digan la verdad señores nacionalistas digan que la selección vasca conllevaría una liga de tercera de tercera división por tanto su planteamiento no tiene encaje legal no es la historia vasca y hundiría el deporte de élite

grandes equipos entonces por qué defienden estos

por qué quieren esto de una selección que compita al margen o contra españa por qué están en estas ustedes la verdad de lo que está detrás de su propuesta es usar el deporte

utilizar el deporte para hacer política una manera de actuar por cierto y no se ofendan que siempre han utilizado especialmente las dictaduras los régimenes no democráticos

sobre todo con el fútbol y las masas y ustedes con propuestas como estas

para sus intereses políticos contaminar el deporte con sus pretensiones identitarias con su pueblo

en su intervención por eso acabo diciéndoles

a unos y a otros que dejen en paz a los deportistas

más con esta cuestión no vaya a ser que sus actitudes se acaben pareciendo a los métodos de quien convocaba el uno de mayo unos partidos

muchas gracias presidenta yo voy a ser más breve y menos divertido que el señor basagoiti

ciertamente no podemos engañarnos señor basagoiti esta es una reivindicación

clásica del nacionalismo a la que obviamente nosotros vamos a oponer es una reivindicación nacionalista defendida con argumentos nacionalistas es decir sin ningún tipo de argumento más que el deseo

vasca de fútbol o del deporte que sea en fin nosotros no tenemos ningún problema aunque tampoco nos sobre tiempo

asuntos simbólicos y lo que cada grupo considere aunque se planteen como en este caso como se ha dicho cosas imposibles

el nacionalismo únicamente voy a decir que nosotros hemos presentado una enmienda de totalidad

al país vasco y por otro lado que se inste al gobierno vasco a gestionar la presencia de selecciones españolas de otras disciplinas deportivas para que disputen sus competiciones en localidades del país vasco esta es la enmienda que nosotros hemos presentado lo cierto es que la selección española de fútbol no juega en euskadi desde el treinta y uno de mayo de mil novecientos sesenta y siete

un rasgo de normalidad sería conseguir que después de tantos años de cuarenta y cinco años la selección de españa

caso en euskadi de modo que los aficionados vascos a este deporte pudieran disfrutar de su presencia el país vasco es un lugar donde el fútbol tiene una gran tradición

se merecen poder recibir y ver a su selección jugar en tierras vascas efectivamente en el año dos mil nueve el día dieciséis de noviembre del año dos mil nueve planteamos una propuesta con estas características salió aprobado con los votos del grupo socialista y del grupo popular dos años después de que se aprobase

una pregunta a la consejera de cultura para saber qué se había hecho para facilitar o impulsar la presencia de la selección española de fútbol en euskadi y contestó lo siguiente y es literal la presencia de las selecciones españolas

entre las federaciones autonómicas y españolas es decir no se hizo nada volvimos a insistir tiempo después tampoco se hizo nada y es

que es razonable pedir que cuarenta y cinco años después la selección española de fútbol o de otros deportes pero especialmente la selección española de fútbol por su simbolismo pueda jugar en euskadi pueda jugar en una parte de españa

de que la selección española de fútbol tenga que jugar obligatoriamente en euskadi todos los años pero lo cierto es que tampoco puede estar prohibido como parece que está y lo cierto es que han pasado cuarenta y cinco años desde la última vez que jugó y creo que esto antes o después se acabará y tendremos por aquí jugando a la selección española de fútbol y todos los aficionados que quieran asistir podrán hacerlo

sin mayores polémicas votaremos a favor de nuestra enmienda de totalidad y a favor también de la enmienda planteada por el grupo popular

compañeros parlamentarios nos encontramos

que en el fondo lo que pretende es utilizar el deporte como seña de identidad de euskadi en vez de preocuparse realmente por el deporte y por los deportistas vascos en el fondo de la cuestión de esta proposición no de ley se traduce fundamentalmente en un problema normativo y judicial el origen de este asunto como ya he dicho el portavoz del partido popular se sitúa en el artículo dieciséis punto seis de la ley catorce barra mil novecientos noventa y ocho del once de junio del deporte del país vasco según el que se reconoce

del deporte federado vasco en el ámbito estatal e internacional es un artículo mencionado de esta mención que fue recurrido por el presidente del gobierno el señor aznar ante el tribunal constitucional

que lo que hizo fue paralizar este artículo y no entró en vigor sin embargo el año pasado el tribunal constitucional resolvió definitivamente diciendo que la ley vasco del deporte es legítima en todos sus aspectos incluido este artículo dieciséis

amparan en este artículo para salir en defensa de la oficialidad de las selecciones deportivas vascas

y su derecho a competir internacionalmente en campeonatos lo que no tienen en cuenta porque no les interesa es lo que dice esa sentencia del tribunal constitucional

hay que entenderlo de acuerdo con el fundamento jurídico número once que le leo a continuación en conclusión el primer inciso del artículo dieciséis punto seis de la ley del deporte del país vasco según el cual las federaciones vascas

es constitucional siempre que se trate de deportes en los que no existan federaciones españolas y en ningún caso se impidan o perturben las competencias del estado de coordinación

el fundamento jurídico número once de esta sentencia y desgraciadamente aunque no les guste sí hay selecciones deportivas españolas de todos los deportes salvo herri kilorak y la federación deportiva vasca

y pelota que han decidido libremente no estar incluido en estas federaciones el resto

con absoluta normalidad en las competiciones que organizan dichas federaciones

en ningún caso dicha representación en el ámbito internacional aparte de que son las propias federaciones las que tienen capacidad para decidir libremente si quieren estar inscritas en las federaciones superiores y en este caso sí lo están por eso los socialistas consideramos que esta cuestión que ustedes plantean no es un debate que realmente se esté dando dentro del mundo del deporte ni dentro de las federaciones deportivas

si quieren inscribirse o no y en este caso sí lo están le vuelvo a repetir la federación deportiva vasca

han decidido no estar porque tienen la libertad de no estar

actualmente es imposible la oficialidad de esas selecciones vascas y por eso no quiere decir que los socialistas vascos estemos en contra de que la selección vasca participe en competiciones porque como décimos en nuestra enmienda de totalidad creemos que debemos apostar

un mejor nivel del deporte vasco que permita una mayor presencia de nuestros y nuestras deportistas en competiciones

económicamente por eso nos sorprende que la enmienda

la misma que se presentó en la legislatura pasada excluyendo el punto número cuarto que es el apoyo económico nosotros creemos que también hay que hacer ese apoyo económico a las federaciones vascas además también lo que nos sorprende es que ni tanto eh bildu ni el partido nacionalista vasco solicitan en su proposición no de ley o en la enmienda la actualización

que recoja el reconocimiento absoluto de la autonomía y por tanto la oficialidad de las selecciones deportistas vascos

y yo creo que tanto ustedes como el partido socialista sabemos por qué esto

de participar en competiciones nacionales e internacionales bajo la representación de su correspondiente federación española en el fondo pena que pretendan utilizar el deporte de esta manera en vez de preocuparse realmente de apoyar a los clubs deportivos y a las diferentes entidades para que puedan participar

restringe nuestra capacidad de representar el deporte federado vasco en el ámbito estatal e internacional en muchas ocasiones

y también en este parlamento se nos ha recordado que nuestras reivindicaciones no eran posibles igual que hoy aduciendo que había que respetar las leyes y normativas haciendo hincapié en todo momento en el recurso interpuesto en el tribunal constitucional el cual ha dictado sentencia catorce años después con el siguiente perjuicio para las federaciones vascas a las que se les ha negado sistemáticamente

borondate hauek aipatuz voluntad de las propias federaciones vascas a decidir libremente con qué selecciones y en dónde quieren competir

voluntad de las federaciones internacionales para reconocer y admitir a las federaciones vascas sus decisiones

la voluntad del entonces gobierno vasco hoy las cosas han cambiado el director de deportes en su comparecencia en el parlamento esta misma semana decía gure helburua euskal selekzioak indartzea da

señor basagoiti le tengo que reconocer que usted es un buen profesor de historia y lo que usted dice

lo que supuestamente hacemos nosotros es lo que vosotros hacéis en españa

lo que nosotros no queremos hacer eta aipatu duzu guk hemen aipatu ditugun

andrea yo creo que no se puede confundir a la gente y no se puede comparar la situación de gran bretaña y del reino unido con la que tenemos aquí en euskadi hay una costumbre de hace decenas de años de jugar de manera separada absolutamente respetada y con condicionantes de nunca se han producido en la historia

ni en el desarrollo de sus ligas profesionales ni en el desarrollo de sus selecciones y no pierdan nunca el concepto de que cultura democrática

puntual en ese momento es que lo que hace falta es respetar las normas

es respetar lo aprobado gracias a lo que emana de la voluntad popular

es también no usar el deporte y especialmente los deportes para pasiones partidarias o para pasiones identitarias cosa que este portavoz no ha hecho en su primera intervención y tampoco va a hacer en su segunda intervención y sobre todo

no es verdad que sea todo voluntad me da igual si unos quieren selección de euskal herria y otros de euskadi pero no es la vida la política y la verdad no es solo voluntad

podrían hacerse de manera muy extraña lo que vayan a aprobar hoy aquí o puedan acordar no acordar o aprobar selección de euskadi selección de euskal herria no va a ningún sitio porque no se trata solo de voluntad

o diez votos más de lo que podemos votar luego si la vida fuese voluntad si la política fuese voluntad si el parlamentarismo fuese voluntad si la ley solo fuese voluntad pues a lo mejor un día podrían aprobar aquí que messi es vasco si es voluntad

porque además de jugar en los partidos de la selección vasca en navidades

pero eso no es verdad no es real y no puede ser y nunca va a ser eskerrik asko

en mi primera intervención creo que este debate no existe realmente en el mundo deportivo ni en las federaciones ni entre los deportistas y usted dice señora ubera las instituciones debemos ir juntos con las diferentes entidades pero ellas quieren venir con nosotros quieren hacer este cambio

preguntemos a los deportistas preguntemos a xabi alonso a ver si quiere jugar o no en la selección española de fútbol

le preguntamos si se arrepiente de haber ganado dos eurocopas

si le quema el dinero que ha ganado por las primas le preguntamos porque el dinero ha venido del estado le preguntamos a ver si no lo quiere y pregunta que a mí me gustaría hacer y en el caso

en el caso que llegáramos a ganar un mundial por ejemplo sí

en relación por ejemplo a los olímpicos podemos mirar los olímpicos que han ido a las últimas olimpiadas y han percibido medallas si no tienen el apoyo las ayudas que le da el gobierno competirían en las mismas condiciones que cualquier otro deportista yo creo que no o sino

a ver si tendría el mismo palmarés deportivo si hubiera jugado con la selección de balonmano vasca en vez de

le hubiéramos preguntado pues seguro que no entonces

fíjese que lo he pensado que a quien hacen ustedes un favor

en relación a la comparecencia que ha mencionado el director

poco tiempo el mismo director de deportes nos informó cuál es el entramado

y pregunto yo la mayoría de esas federaciones veintiuno en concreto tienen menos

esas federaciones iban a tener la misma capacidad que una selección española de lo que sea de cualquier deporte

entonces ustedes presentan una enmienda a la totalidad y una proposición de ley

y se lo he dicho anteriormente y se lo vuelvo a repetir en ninguno de los dos documentos viene la solicitud de la modificación de la ley del deporte en concreto del artículo dieciséis por lo tanto

creo que su primer discurso y esto va para el partido socialista también el segundo creo que ha sido más de chiste que de otra cosa creo que estamos tratando algo más

para euskal herria creemos que para defender cada

no hay que menospreciar la otra señor basagoiti y usted creo con el relato que ha hecho aquí del ranking de equipos

con el recurso algunas federaciones se les ha negado sistemáticamente este derecho

sin preguntarles como decía el señor zaballos si quieren participar o no

a estas federaciones el daño causado durante catorce años euskal herria bilduri

beraz ez dugu gauzak kontraesanak esaten al partido socialista decirle que entiendo que sigue en la misma línea que el gobierno del año pasado

sin priorizar la oficialidad de las selecciones como lo he dicho en mi primera intervención y decirle también que no se preocupe por las ayudas y primas del gobierno que el actual gobierno tiene la voluntad suficiente para ayudar